en la sesión plenaria de ayer el parlamento elegía con un amplio consenso tanto a los parlamentarios como a los expertos que lo representarán en el consejo de dirección de instituto de la memoria a falta de que las nuevas diputaciones y eudel

el instituto se inaugurará oficialmente el día diez de noviembre día de la memoria en euskadi poniendo de esta manera un broche de oro a esta iniciativa este nombramiento coincide en el tiempo con otras iniciativas también relacionadas con la paz y la convivencia

en concreto en las últimas semanas se ha anunciado la elaboración de un proyecto de ley sobre víctimas de abusos policiales con el objetivo de reconocer y reparar institucionalmente este colectivo y al mismo tiempo evitar posibles inseguridades jurídicas en el necesario reconocimiento oficial a estas víctimas este anuncio recibió recientemente

aprobando una proposición no de ley con un consenso desconocido hasta la fecha

el gobierno vasco celebró dos jornadas de trabajo con las asociaciones de víctimas y víctimas del terrorismo de todo el estado el acto de donostia en el que usted señor lehendakari

extraordinariamente valorado y reconocido por muchas víctimas y por sus principales asociaciones frente a toda esta actividad la responsabilidad de este parlamento sigue estancada

ponencia que debiera estar desde hace tiempo impulsando y haciendo seguimiento del plan de paz y convivencia bitartean eusko jaurlaritzak

hobetze aldera nuestro compromiso es dar cumplimiento al plan de pan y convivencia primero en el ámbito de la clarificación del pasado antes de final de año contaremos con el informe sobre el impacto de la amenaza

también el estudio que esta universidad desarrolla sobre el tema de la extorsión el instituto vasco de criminología finalizará para verano del próximo año la investigación sobre la tortura los días treinta y treinta y uno de octubre organizaremos

segundo en el ámbito de las políticas públicas de víctimas continuaremos con las políticas de asistencia reparación y reconocimiento a las víctimas el consejo de gobierno aprobará en octubre el documento batera que a modo de compromiso dará continuidad al acto que celebramos el cinco de junio en las jornadas sobre víctimas del terrorismo y sociedad

una ley de reconocimiento a víctimas no reconocidas de violaciones de derechos humanos causadas por abuso de poder uso ilegítimo de la violencia y violencia parapolicial tercero en el ámbito de las políticas públicas de memoria puesta en marcha

colaboración con el proyecto de memorial de víctimas del terrorismo desarrollo de las doce líneas de actuación del programa base de prioridades en materia de memoria histórica cuarto política penitenciaria y de reinserción desarrollo de las propuestas zuzen bidean tratando de recuperar el estado de normalidad penal y penitenciaria elaboración para junio del próximo año de un modelo detallado de reinserción legal y viable

políticas sociales de convivencia experiencia de participación plaza de la memoria promoviendo el consenso de las diputaciones forales y los ayuntamientos ampliación del acuerdo gizalegez con los agentes educativos

lekutik eskerrik asko lehendakari jauna simplemente para reconocer el trabajo que está realizando el gobierno en este campo que está cumpliendo los compromisos adquiridos

y reiterar el compromiso de este grupo con el plan y con los planes

e insistir en la necesidad de que los partidos políticos representados en este parlamento seamos capaces de estar a la altura de los retos y de
hacer los trabajos que tenemos encomendados y poner en marcha otra vez la ponencia de paz y convivencia nada más gracias eskerrik asko iturrate jauna

atropello contra el derecho de reunión pacífica el derecho de actuación política social o si se quiere contra el derecho de libertad de expresión

golpeando con razonamientos intereses o con actitudes que consideramos que no tienen cabida ni en este país ni en esto que venimos a denominar nuevo tiempo pero que lamentablemente parece que además viene para quedarse porque esto precisamente parece que viene con carácter

una apariencia como digo sistémica y generalizada no son hechos aislados sino que vienen a demostrar una situación que podríamos calificar de involución nuevamente con el membrete de la justicia española un verdadero expolio que afecta es verdad al esfuerzo colectivo que se han hecho en estas herriko tabernas a sus propietarios a cientos de trabajadores a miles de usuarios pero también a ciudadanos que han convivido

confieren en algo que nuevamente va a ser expoliado además

y el año dos mil tres se construyó efectivamente la tesis de que eta era eta y su entorno que derivó luego en el todo es eta y sobre esta base se articularon

límites difusos en las conductas tipificadas como terroristas y eso dio lugar a situaciones y consecuencias injustas que hemos denunciado y también

el gobierno vasco o el lehendakari no compartan el sentido y el origen de determinados procesos judiciales y otra muy distinta

de las consecuencias de sus errores en el pasado de sus errores

al gobierno vasco en relación a lo que pueda ser una responsabilidad de las instituciones yo no obstante insisto la sociedad y las instituciones vascas

haya sostenido durante décadas el apoyo a la violencia se les exigió de forma mayoritaria firme y clara que acabarán con ello y miraron para otro lado señor arzuaga y esto yo creo que tiene que mover

en este planteamiento de pregunta al gobierno sobre los procesos judiciales sobre los que ya nos hemos pronunciado

incluso también la interpretación que desde nuestro punto de vista

procesos judiciales yo quiero recordar la sociedad y las instituciones vascas tampoco somos responsables de las políticas de excepción y las modificaciones legales del gobierno español hemos manifestado nuestra oposición a estas políticas y lo seguimos haciendo bueno sería en todo caso señor arzuaga que además de manifestarnos quienes puedan tener

alguna posibilidad más de moverse como son ustedes en la izquierda abertzale

supuestamente informativo que se ha dado por parte del servicio público e i te be al evento gure esku dago está en total contradicción con lo que dice el artículo tres de la ley de creación del ente e i te be que leo textualmente la actividad de los medios de comunicación social cuya titularidad corresponda a la comunidad autónoma se basará en los siguientes principios

imparcialidad de las informaciones b la distinción y separación entre información y opinión requiriendo esta última la identificación de quienes la manifiestan

y no hay objetividad cuando la radio televisión pública planifica una cobertura previa en el día y posterior que excede la importancia del acontecimiento sobre el que se quiere informar esa cobertura responde exclusivamente a una decisión política

de la convocatoria de una organización social esta decisión tuvo como resultado un publi reportaje en el que se obvió cualquier distinción entre información y opinión que los periodistas sin atribuir a ninguna fuente den por sentado que es y entrecomillo

que se diga también entre comillas la ola es imparable o que se subtitule con el lema cosiendo un sueño

por eso preguntamos a la consejera si considera que el tratamiento informativo ofrecido por e i te be

con los principios generales recogidos en el artículo tres de la ley de creación del ente e i te be eskerrik asko unzalu jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andreak dauka hitza

de ofrecer una cobertura informativa desproporcionada y excesiva a la iniciativa gure esku dago

tuvo usted ocasión de ver la prensa el día veintidós de mayo yo sí y recuerdo perfectamente porque he corroborado antes de proceder

que el acontecimiento que usted rebaja a una simple convocatoria de una organización social apoyada por un único partido fue portada de todas las cabeceras de prensa que se editan en el país vasco noticia que adquirió un desarrollo de entre cuatro y diez páginas en los diarios de vocento
grupo noticias de gara y de berria isiltasuna mesedez incluso el mundo y abc se hacen eco de la noticia

sí me leí el día veintidós los titulares y muchos de ellos decían que era y comparaban el evento del domingo pasado con el de hace unos meses y decía que había rebajado muchísimo afluencia al evento eso es lo que se quedó en la mayoría de los titulares de los periódicos pero yo

de ese evento no solamente el día en que se produjo sino previamente y posteriormente y esto es lo que desde nuestro punto de vista ha sido desmesurado

es cuando se vierten opiniones por parte de los periodistas

pero le voy a repetir los tres ejemplos que le he dicho usted cree que es dar opinión o no es lo que le estoy preguntando si

como elemento informativo sin decir que es el lema

del evento o que es la idea que tiene alguien que ha organizado el evento

que es un lema es un lema que no tiene contenido

no está dando esa cobertura y está identificándose con ese lema

la ciudadanía ya está respondiendo señora consejera sabe que etb está bajando la audiencia estamos en una media de un ocho por ciento de audiencia en etb

este día estos especiales tuvieron un cinco coma cuatro por ciento de audiencia en etb

y creo que en el trasfondo de su pregunta cuestiona la proporcionalidad también la proporcionalidad en los medios siempre es una cuestión de debate porque no es una ciencia cierta es una opción que las direcciones de los medios ejercen con profesionalidad y honestidad atendiendo a los criterios propiamente periodísticos y de interés general dena den

lo sabe perfectamente que dicho programa acogió un debate político plural además en él se recogieron también opiniones de diversas personalidades del ámbito social y político

en todo caso señor unzalu la relación de interlocutores que participaron

en dicho programa es la mejor muestra de que e i te be respeta la pluralidad de la sociedad vasca eskerrik asko uriarte andrea

el real decreto setecientos dos barra dos mil trece de treinta de septiembre modificaba el decreto ciento ochenta y tres barra dos mil cuatro que regula la tarjeta sanitaria individual dicho decreto establece el contenido de las tarjetas individuales

a pesar de dicho pronunciamiento que era conocido por el gobierno vasco el departamento de salud del gobierno vasco siguió adelante con un concurso para elaborar doscientos cincuenta mil tarjetas sanitarias con un coste

con dinero de todos igual que la etb con dinero de todos sin respetar el contenido establecido por todo ello se solicita y solicitamos señor consejero que nos responda esta cuestión

eludir como ha hecho en esta ocasión deliberadamente el cumplimiento de la normativa vigente sobre estas tarjetas individuales sanitarias y en concreto también el pronunciamiento del tribunal supremo

lehendakari jauna egun on guztioi señora garrido el departamento de salud

así como el pronunciamiento dictado por el tribunal supremo ahora bien su pregunta me permite exponer el contenido de dicha norma el real decreto setecientos dos barra dos mil trece que ha venido como usted bien ha dicho a modificar

tarjeta que acredita la identidad y facilita el acceso a las prestaciones tanto en la sanidad pública vasca como en la sanidad del resto de las comunidades autónomas

entre los que figuran identidad institucional de la comunidad autónoma rótulo del sistema nacional de salud de españa y tarjeta sanitaria

emisora de la tarjeta nombre y apellidos del titular de la tarjeta y código de identificación personal único del sistema nacional de salud así mismo regula las características específicas

se acordaron de que en euskadi conviven dos lenguas oficiales y no es que olvidaran el contenido de nuestro estatuto de autonomía olvidaron hasta la constitución española

reconoce que las lenguas oficiales de las comunidades autónomas serán oficiales de acuerdo a sus estatutos pues bien señoría

los datos básicos no contemplaban el uso del euskera se nos respondió que ya había unas leyes

está presentado y adjudicado antes de la comunicación de la sentencia eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna garrido andrea zurea da hitza

señor consejero ustedes conocían el contenido de la sentencia y en cualquier caso me parece

y sacar un concurso en cualquiera de los dos casos mal mire señor consejero ustedes saben que en el reverso de la tarjeta pueden poner lo que quiera usted sabe cuál ha sido el pronunciamiento y la sentencia del tribunal supremo que es

competencial en absoluto y ustedes han desatendido la normativa vigente y las resoluciones judiciales porque han seguido adelante con un concurso

a todos los vascos este real decreto acordado en el seno del consejo interterritorial donde se le dio el visto bueno por parte de esta comunidad autónoma

a ese decreto que ahora ha corroborado la sentencia del tribunal supremo y ustedes señor consejero ha desoído el contenido de la sentencia que corrobora como le digo la referencia al sistema nacional de salud de españa y este gobierno como le decía aun conociendo

sin el rótulo han hecho un gasto inadecuado adquiriendo esas nuevas tarjetas sin respetar la normativa vigente destinando ese importe

para sufragar la etb en la que ustedes continuamente hacen propaganda de su gobierno y de sus intereses partidistas también

que tiene que cumplir esa normativa de forma escalonada en cinco años hasta el dos mil dieciocho por lo tanto usted va a tener luego que cumplir esa normativa y está tirando el dinero

malgastando como le digo el dinero de todos los ciudadanos vascos

no tiene recorrido desde luego señor consejero no estamos para despilfarrar de todos por un capricho una vez más de este gobierno ustedes tienen una previsión que además ha dicho que va a cumplir por lo tanto dinero por ahora tirado a la basura

dejara sus obsesiones particulares al margen y que se centrara en mejorar la atención sanitaria de todos los ciudadanos vascos

que nos hacen perder el tiempo a todos y a usted le despistan de su cometido

desde luego no lo hicimos porque plantee que debe existir los datos básicos de identificación

recurrimos el real decreto porque desde este gobierno compartimos la necesidad de códigos de identificación personal dentro del proceso de normalización y también compartimos que haya elementos para facilitar la intercomunicación o interoperabilidad

pero lo compartimos tanto para el ámbito estatal como para el ámbito de la unión europea circunstancia que parece que al gobierno de madrid no le preocupa además mire nos parece un exceso que no corresponde al estado llegar al extremo de imponer que la letra tenga que ser

negrita del número nueve que tenga que tener la imagen a la derecha la fotografía a la izquierda todos ellos aspectos de gran

que dicho real decreto nos impide ejercer nuestra soberanía para fijar el contenido de las tarjetas sanitarias en euskadi cuando tenemos la tarjeta sanitaria más antigua del estado y no nos negamos a respetar lo que entendemos debiera ser el contenido mínimo fijado por la norma estatal evidentemente y como siempre hemos hecho acataremos el fallo y los próximos concursos de emisión de tarjetas ajustarán su contenido pero acatar y cumplir no significa que pensemos que definir como norma básica determinados aspectos de una tarjeta sanitaria

gracias presidenta buenos días a todas y a todos señor lehendakari

a una farsa política y a un acto impresentable de hipocresía política se eligieron por este parlamento a los miembros del tribunal vasco de cuentas públicas

eligieron y constituyeron un tribunal político para que fiscalice las actuaciones de los políticos de este modo el tribunal vasco de cuentas públicas seguirá como hasta ahora y cómo está el tribunal vasco de cuentas públicas está tomado ocupado por los diferentes partidos políticos y nosotros pensamos que esto hay que cambiarlo radicalmente para que pueda realizar correctamente su función y su trabajo salvo upyd que piensa que los miembros del tribunal vasco de cuentas públicas no deberían ser elegidos por los grupos políticos y que hay que

todos los demás partidos han tratado de colocar a los suyos dentro del tribunal desde dentro puedan defender sus propios intereses de partido y esto es lo que proponemos nosotros cambiar y esta es la farsa en la que usted también participó ayer

absolutamente impresentable y va en contra de la necesaria profesionalización y modernización del tribunal vasco de cuentas públicas entre sus miembros estará el exdiputado general de bizkaia el señor bilbao en un ejercicio descarado

del partido nacionalista vasco con el apoyo del partido socialista en un tribunal que tiene como función principal la fiscalización de las distintas instituciones vascas ustedes le han buscado una salida laboral al diputado

puerta giratoria claramente algo absolutamente lamentable

al tribunal vasco de cuentas públicas y esto va en contra de la necesaria profesionalización del tribunal vasco de cuentas públicas los distintos grupos han protestado por este hecho pero todos ellos han tratado de colocar a los suyos y al mayor número de suyos posible esta es la hipocresía como decía al principio usted participó en esta farsa considera a día de hoy señor lehendakari que podemos decir que el tribunal vasco de cuentas públicas es un tribunal profesionalizado que puede realizar perfectamente

los que están dentro son personas elegidas por los distintos partidos políticos para que defiendan sus intereses considera que la incorporación del señor bilbao garantiza

legebiltzarburu andrea en primer lugar señor maneiro y tal y como usted ha dicho

esta es una decisión aprobada donde procede y como procede es una decisión del parlamento vasco del que usted forma parte y ha sido

la ley uno barra mil novecientos noventa y ocho que regula el procedimiento requisitos

incompatibilidades y prohibiciones de acceso al tribunal de cuentas públicas usted ayer tuvo la oportunidad de posicionarse en relación a esta decisión y lo hizo diciendo que no iba a participar en esta farsa que ha utilizado esta expresión hoy en tres ocasiones

o por lo menos del hemiciclo y también hicimos el resto de parlamentarias y parlamentarios de esta cámara nuestro posicionamiento ofreciendo un amplio respaldo tanto al informe previo de la comisión de incompatibilidades como al nombramiento de todas y todos los miembros del tribunal incluido el señor josé luis bilbao la decisión de esta cámara cumple el espíritu y la letra de la ley

son conocedoras del debate suscitado y son conscientes de su responsabilidad para dar cumplimiento a la labor encomendada por este parlamento

en que la actitud responsable de quienes forman parte del tribunal de cuentas públicas garantiza su independencia y profesionalidad en la gestión lo mismo que en ocasiones anteriores señor maneiro eskerrik asko

sí gracias señor lehendakari efectivamente fue una decisión tomada por este parlamento y en mi opinión una decisión absolutamente vergonzosa

porque efectivamente lo que se pretende es colocar dentro del tribunal vasco de cuentas públicas

todos los grupos políticos sin excepción y efectivamente así es como ha funcionado el tribunal durante los últimos tiempos su credibilidad está claramente lastrada está laminada y va a seguir estándolo ha habido

le falta la modernización necesaria y su profesionalización es un tribunal de cuentas claramente politizado y por lo tanto hay que cambiar el modelo

y ustedes votaron en contra de la mano del partido socialista para qué para seguir controlando el tribunal vasco de cuentas públicas desde dentro y no pueda realizar

ese tribunal y quieren que esto continúe así en el futuro

radicalmente para profesionalizarlo para modernizarlo para despolitizarlo y esto evidentemente

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro le reitero que el procedimiento seguido se ha ajustado plenamente a los principios de la ley y usted aunque solo como dice seguirá haciéndolo usted tiene pleno derecho a plantear su modificación mire efectivamente la elección de josé luis bilbao contó también con mi voto favorable sí esta decisión responde a un consenso amplio que permite conformar un equipo que va a dar la estabilidad y continuidad necesarias a esta institución

por este parlamento sin tener en cuenta la profesionalidad de toda la institución también es reducirlo a lo que es la responsabilidad de las personas elegidas sin

en todo caso josé luis bilbao ha demostrado durante años su capacidad y saber hacer en las responsabilidades institucionales que ha asumido señor maneiro cuenta con preparación y conocimiento profundo en materia de gestión presupuestaria financiera y control del gasto público

y entrega al servicio público ahora ha sido elegido por esta cámara para formar parte del tribunal vasco de cuentas y como lehendakari no puedo más que reconocer su experiencia y trayectoria profesional en la gestión pública

con mi confianza en la seguridad de que como el resto de las personas elegidas actuará siempre con plena independencia y a los hechos me remito en lo que ha sido la actuación también de los diversos y diferentes miembros del tribunal vasco

lehendakari los socialistas vascos consideramos que lo acordado el pasado dieciocho de junio por este parlamento aprobando la ley de vivienda es un hito

el grupo que apoya al gobierno y el propio gobierno que usted preside no hayan entendido la trascendencia de esta ley y la necesidad de haberse implicado a fondo de verdad

pero esperamos ahora su sincera implicación y cuando décimos sincera lo décimos en su acepción completa

va de suyo que el gobierno debe cumplir y hacer cumplir la ley es además lo que juran o prometen todos sus miembros para acceder al cargo

he de reconocerlo que nada más finalizar la votación el consejero ángel toña no se limitará a esa obligatoriedad en el cumplimiento y utilizará la expresión hacer suya esta normativa que hablara de lealtad con lo dispuesto por esta cámara lo que no nos gustó nada

en otras partidas sociales y la inhibición apuntada en caso de que hubiese algún recurso que dificultará la ejecución de la ley nos disgustó también

en una ley que ha llevado dos años largos de tramitación parlamentaria con continuas peticiones de aplazamiento para alargar el tema

garantizar derechos a la disponibilidad presupuestaria deja muy mal ese talante social cristiano del que dicen

porque entendemos los socialistas que los derechos se consolidan y se garantizan independientemente o sin tener en cuenta solamente

nos pareció francamente lamentable el remate de la vice consejera ese fin de semana utilizando mentiras tengo que decirlo así y medias verdades que recordaban a las más que lamentables declaraciones que en su día hizo el portavoz de este gobierno en aquella iluminada jornada en la que habló efecto de llamada mundial

aunque fuera una clamorosa falsedad a nada que se leyera la ley

sobre cuál va a ser el desarrollo reglamentario de la ley y una vez más

le voy a leer su propio código ético un artículo que ya hemos tenido que repetir

once punto seis así mismo la honestidad en el ejercicio del cargo público además ser capaz de transmitir veracidad credibilidad y no recurrir al engaño o a la distracción o al encubrimiento de los problemas a resolver

acudió al engaño y a la distracción cuando intentó sembrar y eso era su intención claramente una alarma social injustificada con la frase señalada en esa rueda de prensa y que se podía haber ahorrado perfectamente y la vice consejera mintió

mintió cuando este sábado dijo en dos periódicos

como ya dijo el consejero en febrero del dos mil trece estábamos trabajando en el proyecto de ley de vivienda pero no nos dio tiempo suficiente y a los tres meses el partido socialista presentó el que era el texto del gobierno vasco y en el que se invirtió muchísimo dinero en la redacción creo que ya vale de jugar a trileros

cuando compareció en este parlamento para explicar su calendario legislativo adelantó su intención de presentar dieciséis leyes ninguna de ellas era la de vivienda

y usted dijo que estaban mirando a ver qué hacían y añadió otra cosa que estaba abierto a debatir propuestas de los grupos y a no tirar a la basura proyectos de la etapa anterior

que ya estaban elaboradas por el anterior gobierno pero esta no sencillamente porque no les interesaba porque legítimamente no entendían que hubiera que regular este derecho subjetivo que nosotros sí entendíamos que había que hacerlo así

una semana después de que usted confirmará en el parlamento su falta de interés en esta ley que se corroboró con el criterio contrario que emitió además su gobierno

y con su ausencia nuevamente en el calendario legislativo presentado en junio y eso sí que era tirar el dinero a la basura porque efectivamente había costado mucho esfuerzo hacer ese proyecto

no voy a hablar del dinero público que costaron las enmiendas presentadas por el partido nacionalista vasco veintiuno mil quinientos treinta y ocho euros acreditados por el pago de un informe a una empresa privada

a ciento noventa euros la enmienda vino a salir esa es la verdad una discrepancia ideológica me parece legítima ustedes no creen en el derecho subjetivo

los representantes del pnv la tenía ya el proyecto del anterior gobierno además de todas las bendiciones de los informes locales correspondientes y en esta además a petición del pnv que confirmaba las previsiones iniciales y a instancias del gobierno poco después

memoria económica así que es mejor que no hablásemos con tanta ligereza no vamos a entrar en este momento ya a discutir las cuestiones de fondo de la ley

ya hemos hecho el debate y su gobierno asume la mayoría que se ha producido lo que le pedimos ahora al lehendakari es que haga de verdad suya que nadie de su gobierno aliente nuevos fantasmas y que se pongan a trabajar técnicamente en todo lo que sea necesario para garantizar que nadie se quede en la calle

que su gobierno se emplee a fondo como en otros casos en la defensa de nuestra capacidad competencial como lo ha hecho ya en otras veintitrés ocasiones y donde sabe

y por eso queremos conocer cuáles son las intenciones del gobierno para garantizar cuanto antes el desarrollo reglamentario que garantice los derechos reconocidos a la ley de vivienda

señor pastor evidentemente soy muy consciente

una ley que ha tardado treinta y cinco años en ser aprobada en el parlamento vasco

y tan consciente soy que usted me pide mi implicación personal

y le expondré no ahora sino también en el proceso

para el debate de la proposición de ley y usted lo sabe señor pastor usted lo sabe pero no voy a entrar en disquisiciones sobre lo que es ni siquiera los aplazamientos de la ley porque de aplazamientos de los proyectos de ley podríamos hablar también largo y tendido no voy a entrar en disquisiciones tampoco

sobre el origen de la proposición de ley es a lo que se refiere también la vice consejera y no en ese campo

en todo caso señor pastor mire no es mi intención reproducir hoy tampoco el extenso debate y las diferentes posiciones mantenidas en esta cámara en relación a la ley de vivienda el gobierno y los diferentes grupos parlamentarios ya hemos manifestado

y en ese sentido hago mías las palabras inmediatamente haber sido aprobada la ley

la ley se ha aprobado y es obligación del gobierno su materialización a través del desarrollo reglamentario pertinente es nuestra ley es la ley de todas y de todos esta es por lo tanto la intención del gobierno y doy con ello clara respuesta

en cualquier caso permítame dejar constancia de que cuando menos dejar constancia de que presentó usted su interpelación el veintidós de junio apenas cuatro días

de su publicación en el boletín oficial del país vasco que se ha producido precisamente hoy este día en el que estamos sinceramente esta urgencia que no

por su parte inmediatamente al que se hubieran aprobado determinadas decisiones en este parlamento

perplejidad esta urgencia en mayor medida cuando usted mismo insisto escuchó las declaraciones realizadas por el propio consejero

hace solo ocho días yo le puedo garantizar que el gobierno no va a demorar la puesta en marcha de los procedimientos necesarios para su desarrollo reglamentario le puedo asegurar que trabajaremos estrechamente con los agentes y con las instituciones afectadas

pero con la misma rotundidad le confirmo que lo haremos desde la perspectiva de garantizar la seguridad jurídica de los pasos que vayamos dando y prueba de esta voluntad es que antes incluso de la publicación de la ley en el día de hoy señor pastor ya se ha constituido y puesto en marcha un grupo de trabajo interno en el gobierno vasco

urgentes a considerar para el correcto desarrollo reglamentario de esta ley este grupo de trabajo es necesario porque como bien sabe usted esta no es una ley

usted sabe que el propio texto de la ley deja abiertas muchas lagunas e incertidumbres que es preciso trabajar las lagunas e incertidumbres más relevantes son económicas

por mucho que usted diga que ha tratado también la memoria económica tiene en ese sentido sus lagunas y por lo tanto es muy complicado conocer los efectos presupuestarios exactos que su aplicación puede conllevar a corto o medio plazo

y por responsabilidad el gobierno vasco va a incorporar esta valoración económica al proceso de elaboración de los presupuestos para el año próximo el año dos mil dieciséis en segundo lugar nos encontramos también con lagunas e incertidumbres constitucionales que evidentemente nosotros defenderemos lo que tengamos que defender

usted es plenamente consciente de que esta ley contiene determinados artículos que afectan o que pueden afectar al estatuto jurídico de la propiedad amparado constitucionalmente y estos artículos una vez publicada la ley hoy pueden ser recurridos ante el tribunal como ha sucedido en otros lugares del estado español algo

sabe también ha sido debatido en el propio parlamento vasco no le niego que me preocupa que pueda suceder también en la comunidad autónoma del país vasco a pesar de que insisto que esta ley contará con la defensa en su caso por parte del gobierno vasco también en los otros ámbitos competenciales que afectan al gobierno vasco en tercer lugar nos encontramos con las lagunas e incertidumbres en relación a la afección municipal le quiero reiterar que esta ley no ha sido analizada por la asociación de municipios vascos eudel no lo ha sido eso sí usted sabe bien que los municipios se van a ver directamente afectados por la aplicación de esta ley tanto en la gestión e identificación de los pisos vacíos

que pueda tener la decisión de dedicar los suelos públicos a vivienda de alquiler beraz pastor jauna ez didazu ukatuko garrantzitsuak direla

todas las materias consideradas cuya mera mención su mera mención ya en sí misma da idea de la complejidad de la tarea derecho subjetivo a la vivienda patrimonio público del suelo depósito de fianzas canon a viviendas deshabitadas alquiler forzoso

por impago de rentas creación de un organismo con el objeto de integrar las diferentes empresas y organismos existentes en materia de vivienda materialización progresiva de la reorientación de la política de vivienda hacia viviendas de alquiler y su repercusión en el resto de políticas actuales de rehabilitación y construcción

sin dilación y espero que con el apoyo de los grupos parlamentarios eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna pastor jauna zurea da hitza

gracias señor lehendakari he de reconocer que hay

de su respuesta no voy a entrar en la voluntad política o no que tuvo su gobierno a la hora de presentar este proyecto que es evidente que no lo hizo

una ley de vivienda me agrada que usted hable de la ley definiéndola nuestra ley pero eso hay que hacerla después verdad no solo un eslogan y me preocupa mucho

su grupo parlamentario usted ha vueltoa referirse también a él sobre los recursos que previsiblemente puedan o no ser presentados ante el tribunal constitucional no por los mismos causas probablemente que fue recurrido el decreto andaluz que no una ley un decreto

las posibles lagunas jurídicas pero eso no quita que se dé la posibilidad y yo quiero volverle a reiterar nuestra disposición a apoyar

que si eso se produce usted defienda la soberanía y la competencia

el gobierno vasco en este caso en cuanto a la ley de vivienda usted me habla de un grupo de trabajo y me parece bien que se pongan a trabajar pero

en una especie de comisiones de esas que se montan para dilatar los temas y con la escusa de la complejidad y de analizarlo con mucha calma y detenimiento la ley no acabe de desarrollarse y el reglamento no acabe

porque eso suele pasar en algunas ocasiones no niego la complicidad

de la ley pero permítame usted que tenga al menos todavía dudas sobre el desarrollo y la rapidez con todas las garantías legales

porque parecería lógico que un gobierno que ustedes en su eslogan definen como el gobierno de las personas

que esta ley responde a un derecho fundamental de las personas el de tener un techo donde cobijarse un derecho tan importante para nosotros como lo es la salud

hacer verdad ese eslogan para que no quede simplemente en eso en un eslogan esto es uno de los derechos que hoy marcan la impronta en el país vasco de lo que es una política avanzada

al resto de comunidades autónomas y va a constituir sin duda alguna

tienen que garantizar su aplicación lo acabará siendo y creo que tenemos que sentirnos orgullosos de que esta haya sido la primera comunidad autónoma el primer parlamento autonómico que ha aprobado una ley de estas características así que señor lehendakari le tomo la palabra

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor pastor estoy acostumbrado a que me tomen la palabra porque para eso la comprometo en cualquier caso yo le reitero que es voluntad del gobierno proceder al desarrollo reglamentario de la ley

y no porque sea la ley del gobierno vasco del partido nacionalista vasco que no habría sido esta es la ley de todas y de todos una vez de que la ha aprobado el parlamento vasco y que como tal le corresponde al gobierno vasco su desarrollo reglamentario le reitero que ya está en marcha un grupo de trabajo interno

de las comisiones para la dilación de los temas que se traten en un grupo de trabajo porque sobre comisiones y dilaciones también en otros ámbitos institucionales podríamos hablar en cualquier caso un grupo de trabajo interno con la presencia del propio departamento competente el departamento de hacienda y finanzas y la participación de lehendakaritza

su segunda intervención en relación al derecho subjetivo reitero y hago constar

que la prestación complementaria de vivienda para todas las personas que no tienen recursos es una realidad aplicada desde el primer día por este gobierno en euskadi

y lo necesitan perciben una prestación complementaria para acceder a una vivienda digna derecho subjetivo en el que creemos el partido nacionalista vasco y su gobierno el gobierno no de las personas el gobierno del compromiso con las personas señor pastor gaur euskadin baliabiderik ez duten

onuradun berriei laguntzeko no partimos de cero señor pastor en lo del derecho subjetivo en cuanto a que se haya aprobado una ley de vivienda hoy en euskadi

sin recursos que están cobrando una prestación complementaria que garantiza el acceso y disfrute de una vivienda digna derecho subjetivo trabajado

del partido nacionalista vasco haga un repaso de nuestro entorno y podrá comprobar que cualquier otra comunidad reconocería que en euskadi las personas más necesitadas

la ley en su disposición transitoria cuarta afirma lo siguiente en el primer año natural a contar desde el día siguiente a la entrada en vigor de la presente ley tendrán derecho a ser beneficiarios de la misma las familias de tres o más miembros que tengan ingresos inferiores

cuatro o más años inscritas como demandantes de una vivienda en etxebide

la materialización de este derecho todas las personas o familias que cumplan este requisito podrán inscribirse para solicitar el disfrute de una vivienda en alquiler

sobre la que no tenemos competencia y no tenemos competencia aunque la hemos pedido en reiteradas ocasiones las reformas a las que se ha sometido esa regulación

no han hecho más que precarizar la calidad de empleo y este gobierno y el partido que lo sustenta se han manifestado contrariamente

lo que no podemos hacer desde este gobierno y entiendo que desde ningún otro es obligar a que no se utilice una normativa que permita crear empleo en condiciones precarias porque se cuenta con las herramientas que así lo permitan hay empresarios que la usan y empresarios que no la utilizan lo que sí podemos hacer desde el gobierno y tratamos de hacer

y la competencia que tenemos es en políticas activas de empleo y a través de las acciones enmarcadas en estas competencias tratamos de fomentar ese empleo de calidad

con el que nos hemos dotado es la herramienta principal que cuenta este gobierno para abordar estas dificultades con las que se encuentran los jóvenes en el mundo laboral

veintidós iniciativas con cuatro ejes de actuación apoyos al emprendimiento joven a la formación dual en tercer lugar fomento de la primera experiencia laboral y cuarto la promoción del talento joven el apoyo

ayudas a jóvenes promotores para desarrollo y puesta en marcha de nuevas ideas empresariales

urrats bat cursos de formación para la economía social

innovadoras en el emprendizaje juvenil estimamos que estas iniciativas pueden apoyar la creación de más de mil empleos directos durante este año el segundo eje al que me he hecho referencia y el de la formación dual y está dotado con más de uno millón de euros en dos mil quince incluye

las dos se ejecutan entre lanbide y el departamento de educación y llegará

a mejorar notablemente su empleabilidad y su salida de la precarización el tercer eje la primera experiencia laboral está dotado

para este año y se desarrolla a través también de distintas acciones lehen aukera

para que los jóvenes sean contratados y no becados la contratación de jóvenes en empresas vascas en el exterior el contrato de relevo

y la orientación especifica a los jóvenes hacia estas líneas y estas acciones entendemos y hemos calculado que

jóvenes en dos mil quince y otros tantos podrían mejorar su empleabilidad y por lo tanto disminuir su precariedad y el cuarto

está dotado con más de siete millónes de euros para este ejercicio y se ejecuta también con distintos

movilidad transaccionales de jóvenes distintas programas para la cooperación con naciones unidas

todo este conjunto de medidas señora zulaika tiene vocación de acción directa transparente y medible en el periodo que nos planteamos destinamos ochenta y seis millónes de euros al servicio del empleo joven en el dos mil catorce dos mil dieciséis

por jóvenes que sean capaces de generar autogenerar dos mil doscientos puestos de trabajo posibilitar primeras experiencias laborales para más de veinte mil jóvenes mejorar la empleabilidad

y dicho lo anterior con todas estas acciones en marcha los datos con los que nos encontramos

nos siguen no gustando y es verdad como ha dicho usted que el consejo vasco de la juventud nos daba a conocer estos datos

que no ganan lo suficiente para vivir el sesenta y seis por ciento no tiene ningún ingreso y los digo yo porque también los dice usted y los hacemos nuestros también porque son datos estadísticos

el cuarenta y cinco por ciento de estos finalizan antes de un año el cincuenta por ciento de los jóvenes aceptan cualquier empleo y el sueldo medio de los jóvenes como ha dicho es

euros cuando el sueldo medio es el doble los sabemos eusko jaurlaritzan ustez sendoa daukagu lanaren bidetik pertsona garatzeko

direla uste dugu eta amaitzeko el acceso al empleo y a un salario digno está incluido entre los derechos sociales que son los que garantizan a todos los ciudadanos sin distinción de nacionalidad

edad clase social el acceso a los medios necesarios para unas condiciones de vida dignas para unas condiciones que contribuyan

cada vez más a las personas sus relaciones y el entorno
en que se desarrollan eskerrik asko toña jauna

ha fracasado y eso es así hay sabemos el presupuesto que se ha dirigido los números de empleo o

podido producir pero vemos que no es suficiente que la precariedad

y que la situación de la juventud vasca es insostenible centrándonos en las políticas activas en lo que tenemos competencia ahí van

llevar acabo por ejemplo en relación también al tema anterior al tema del acceso a la vivienda o al acceso a la

hace dos semanas escasas creo en esta casa planteamos que las personas jóvenes de a partir de dieciocho años también tengan acceso a la renta de garantías de ingreso y no ha salido

se pueden tomar para evitar esa precariedad para evitar la situación en la que viven las personas jóvenes o mediante las contrataciones o las cláusulas sociales en la administración pública

por ejemplo o medidas como en el resto de programas

del gobierno reservar ciertas cuotas también para que un mínimo de contrataciones

o por ejemplo el tema del contrato de relevo algo que está también en nuestras manos pues este año

para impulsar este tipo de contrataciones por ejemplo estas medidas son solo algunas de las medidas que no propone eh bildu que también

el consejo de la juventud están incluidas no son medidas que proponga únicamente eh bildu los jóvenes están pidiendo este tipo de medidas el programa de

también esas personas puedan volver aquí le vuelvo a reiterar

en sus manos está el cambiar las políticas dirigidas a mejorar

la situación de los jóvenes a que cambie de raíz esta situación mucho está en vuestras manos y

con mayúsculas porque no solamente es necesario para la juventud

se requiere dar la vuelta a esta situación eskerrik asko

en relación al empleo juvenil en todo el mundo y no solo entre nosotros destacan el bajo nivel de demanda

mercados de trabajo segmentados que penalizan precisamente a los jóvenes

y la difícil transición del estudio al trabajo y desconocimiento de los jóvenes sobre dónde y cómo buscar trabajo señora zulaika este no es solo un problema nuestro

las consecuencias derivadas de esta situación pueden cuestionar ciertamente el modelo de sociedad que hemos tenido hasta ahora y es que si una generación no coge el tren a tiempo

si se retrasa la edad de acceso al empleo a la vivienda se retrasa el poder iniciar un proyecto de vida independiente

se retrasa la aportación al esfuerzo común de todos y le tengo que decir que aplicar la renta de garantía

no les saca de la precariedad les ayuda pero no les saca de la precariedad el paro no es un frío dato estadístico que a veces lo manejamos nos afecta a la economía nos afecta a la salud nos afecta a nuestra dignidad refleja el vacío y la pérdida de sentido para quienes involuntariamente están en él temporal

hay una tendencia a asumir que un buen trabajo con derechos y buenos salarios es un privilegio de unas minorías solo y que lo normal va a ser prolifere como flexible sin derechos y con salarios bajos estamos hablando de pasar del concepto del empleo para toda la vida

pero tenemos que procurar empleabilidad decente para toda la vida por lo tanto la precariedad laboral que vienen sufriendo los jóvenes nos preocupa

y aún así reconocemos la labor que se viene realizando desde otras esferas

que ha elaborado el documento que usted nos ha mostrado y que nosotros también hemos leído y escuchado donde recoge recetas y recomendaciones para elaborar planes de empleo voy a reunirme con ellos en breve

sí gracias presidenta señor lehendakari el pasado mes de marzo

entre ellas estaba la dirección de la nueva osi de uribe para ocupar ese puesto ha sido designada

al proceso se le nombra por lo tanto a la mujer del consejero de salud considera usted acorde a la ética política de la esposa de un consejero para ocupar un alto cargo del gobierno

al parlamento y a la sociedad qué justificación tiene e insisto no tanto si le parece a usted que sea legal sino si le parece ético

alto cargo mire esta semana el propio consejero ha ofrecido todas las explicaciones requeridas y también el portavoz del gobierno

pero es importante conocer todo el proceso yo le podría hablar desde el año dos mil diez pero usted señor maneiro ya lo tiene que conocer de sobra además

inmersa en un plan de integración de la gestión de los hospitales de referencia con sus comarcas

la organización sanitaria integral es una recomendación de la organización mundial de la salud y se inicia en gipuzkoa por el anterior gobierno en la legislatura pasada en el año dos mil catorce el año pasado se realizaron tres procesos de integración y este año se comenzó con otros cuatro entre ellos el de uribe

para la puesta en marcha también del hospital de urduliz y en todos los casos en todos se han mantenido los equipos preexistentes señor maneiro primero con nombramientos provisionales y convocando inmediatamente las plazas que al ser cargos directivos son de libre designación y en el caso que usted pregunta

se ha aplicado exactamente el mismo procedimiento el mismo

que fue en agosto del año dos mil nueve cuando esta persona fue nombrada directora gerente de uribe por el anterior gobierno que no era del partido nacionalista vasco sin ningún tipo de intervención del actual consejero de salud

del año dos mil doce el uno de enero de este año los dieciocho o los diecinueve directivos de las osi de todas las osi

todas y todos los directivos fueron nombrados con carácter provisional y han concurrido a los concursos de plazas y esta profesional no ha tenido ningún trato de favor respecto al resto de compañeros que estaban en sus mismas condiciones en el proceso de transformación

y que así ha sido en todos los casos de reordenación eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

sí gracias señor lehendakari a pesar de que el consejero portavoz que tiene a su derecha creo que me decía cuando yo hacía la pregunta o terminaba la pregunta que

creo que usted decía de toda la vida esto ha sido así de toda la vida o algo parecido bien a mí esto me parece feo a mí esto me parece poco ético

poco presentable a la sociedad y me parece de muy difícil justificación y creo que estas prácticas las haga quien las haga hay que cambiarlas y yo creo que en este asunto

analizando tres situaciones diferentes por un lado el nombramiento de la mujer de un determinado consejero para que pueda ejercer un determinado cargo

al conjunto de la sociedad con pelos y señales esto es lo primero el segundo que se crea una osi efectivamente no integra nada cuando parece evidente que la configuración o la creación de esta osi no es en absoluto necesaria y ahí tenemos por lo tanto una segunda duda por qué se crea

cuando da la sensación de que efectivamente en este caso concreto no era en absoluto necesario y en tercer lugar creo que merece también que usted explique el sueldo

en relación al sueldo que tenía antes por transparencia por muy legal que sea por muchas veces que se hayan hecho procedimientos semejantes en el pasado o en el presente creo que esto merece una explicación se nombra a esta persona por qué el consejero nombra a su mujer para ese cargo por muy legal que sea nosotros consideramos que es poco ético por qué se crea

cuáles son sus méritos en relación para acceder a este cargo

ya fue nombrada antes como directora provisional con ese antecedente es normal que cuando se convocó el concurso no se presentara ningún candidato más al puesto de libre asignación ya se sabía quién iba a ocuparlo y además era la mujer del consejero a mí estas prácticas no me gustan nada

presentables me parece que pueden ser legales pero que son muy poco éticas y por esto le he preguntado a usted por qué se procede de esta manera

al conjunto de la sociedad a nosotros ciertamente no nos gusta en absoluto eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

el gobierno hoy también ha reiterado que le parece poco ético mire a mí su actitud

porque no atiende no atiende a las respuestas que se le ofrecen le da igual lo que podamos decir

de las osi contempladas o constituidas según el plan establecido

el mismo equipo directivo de cinco personas que estaba cuando se llamaba comarca sanitaria todo el equipo cubre las mismas posiciones con el mismo rango en la organización y la directora gerente señor maneiro

y desde el año dos mil seis al año dos mil nueve como directora médica y después como directora gerente y no nombrada por el consejero actual de salud

no el consejo de salud y cobrando exactamente lo mismo que ahora ningún trato de favor es un proceso que afecta a más de cincuenta directivos este año han sido diecinueve y en todos los casos se ha seguido el mismo procedimiento eskerrik asko

balance breve y conciso del trabajo realizado y logrado y de los éxitos de la actual consejera de seguridad creo que se puede resumir

todo lo que al principio de la legislatura funcionaba mal a día de hoy sigue funcionando mal y todo aquello que funcionaba bien ahora o no funciona

de la actual consejera de seguridad qué le parece a usted

considera que eligió bien cuando eligió a la actual consejera de seguridad para ocupar ese cargo cree que la señora beltrán de heredia es la persona idónea para dirigir

en el departamento se acumulan los problemas se acumulan los conflictos no se aportan soluciones no se soluciona prácticamente nada

están enfrentados permanentemente al departamento de seguridad algo tendrá que ver las actuaciones llevadas a cabo por la consejera alguna responsabilidad tendrá

del trabajo realizado por la consejera durante todo este tiempo eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro balance por balance creo que el mío será más riguroso que el suyo

su capacidad para dirigir el departamento de seguridad en un momento de transformación cuenta con la confianza plena del lehendakari y del gobierno por ese motivo sigue en su responsabilidad la consejera y el departamento en su conjunto

a que los niveles de seguridad en euskadi mejoren paulatinamente balance señor maneiro pues el número de delitos y faltas se redujo en el año dos mil catorce hasta los treinta y nueve coma sesenta y cinco por mil habitantes consolida su tendencia a la baja siete puntos inferior a la media en el estado balance según el sociómetro solo el dos por ciento de la población considera la delincuencia y la inseguridad

y esta cuestión además ocupa el puesto quince en el ranking de preocupaciones personales señor maneiro vivimos un nuevo tiempo y el departamento ha puesto en marcha el plan

acorde al espíritu fundacional y ajustado a la desaparición de la amenaza directa de eta

pero la gestión de la seguridad señor maneiro es mucho más y los resultados son positivos euskadi es más segura y está mejor atendida gracias a la coordinación de los servicios integrados

promovido por esta consejera que obviamente cuenta con toda mi confianza y respaldo eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

sí gracias señor lehendakari usted destaca la capacidad de la consejera para dirigir la organización y efectivamente dice que

y realiza un balance positivo de todo este tiempo yo le pediría que hable usted también de los problemas no resueltos o de los problemas creados durante estos dos años y medio porque también los hay y los hay muchos y son problemas que se mantienen en el tiempo

y el gobierno lo que tienen que demostrar es su capacidad de resolver los problemas y es evidente que esta consejera no tiene esa capacidad de resolver los problemas

algunas cuestiones prácticamente desde que se tomó posesión este gobierno se lleva produciendo un enfrentamiento entre el departamento de seguridad

un desencuentro que lejos de irse apaciguando su intensidad ha ido aumentando

todas las semanas para protestar por la falta de diálogo y por la imposición de diversas medidas

no son las adecuadas para el buen funcionamiento de la policía el viernes pasado todos los sindicatos con representación en el cuerpo anunciaron que aumentan las movilizaciones contra los recortes y el plan horizonte dos mil dieciséis y que durante el verano cambiarán las multas por medidas de educación vial además

al lehendakari a usted le han enviado cartas y a la consejera de seguridad exigiendo que el departamento se siente a negociar las condiciones laborales

usted conoce perfectamente sus reivindicaciones poner fin a los recortes

negociación de una nueva rpt y su consiguiente concurso de traslados la implantación de la carrera profesional negociar un nuevo convenio y la paralización del plan horizonte dos mil dieciséis hay otros asuntos que resumen cómo está el departamento los chanchullos de los nombramientos las irregularidades en el uso de los coches

los centenares de comisiones de servicios o el desmantelamiento de la unidad de investigación estamos por lo tanto ante un cúmulo de decisiones problemas que se mantienen en el tiempo la consejera no está para que usted diga simplemente que su labor ha sido extraordinaria sino para que efectivamente pueda resolver

absolutamente indignados con su quehacer diario los tenemos a las puertas de este parlamento todas las semanas por lo tanto yo creo que lo que debería hacer usted es cesar a la

la consejera está para desarrollar el programa de gobierno como el resto de consejeras y consejeros que tenemos un programa de gobierno

y este gobierno no elude ni oculta los problemas y lo que hacemos es abordarlos y tratar de ofrecer soluciones desde el realismo y desde la voluntad de entendimiento que no es una cuestión exclusiva de este gobierno sino de entendimiento también

esta es nuestra responsabilidad la de abordar los problemas y tratar de ofrecer soluciones mire usted afirma que los agentes se han dirigido por carta

tan cierto como que ya han recibido respuesta razonada y documentada a todas y cada una de las cuestiones planteadas señor maneiro sí desde esa voluntad de entendimiento

han obtenido de la propia consejera en relación al permiso para asuntos particulares y permiso por antigüedad en relación a la negociación del nuevo acuerdo regulador en relación al plan horizonte ertzaintza horizonte dos mil dieciséis

hasta el cien por ciento de las retribuciones en los casos de bajas de incapacidad temporal en relación a la recuperación del poder adquisitivo y de las aportaciones a itzarri en relación a la negociación de la rpt y del concurso de traslados

en relación a la implantación de la carrera profesional acordada respuesta de la consejera a todos los agentes

desde esa voluntad de entendimiento y yo ratifico que desde el ejercicio de la responsabilidad también el departamento de seguridad no cejará en lo que es el esfuerzo constante por abrir líneas de negociación que permitan alcanzar acuerdos para la mejora permanente de las condiciones laborales del conjunto de la ertzaintza esta es la voluntad de

sí señor lehendakari otra pregunta el domingo se celebró en las capitales del país vasco en navarra y en el país vasco francés diversas marchas y concentraciones promovidas por la plataforma

del país vasco y de eso que se llama derecho a decidir contaron con la participación a título individual de destacados miembros del partido nacionalista vasco el partido que gobierna

más destacado su portavoz vio positivo y bueno este tipo de actos y un ejercicio de libertad de expresión mientras que e i te be hizo un notable

sobre el asunto es decir estas actuaciones estos actos recibieron el apoyo entusiasta de la e i te be

específicamente por lo primero por qué consideran ustedes estos actos positivos y buenos positivos y buenos para quién

cosa que nadie está poniendo en cuestión pero otra cosa es que el gobierno salga al paso y diga que efectivamente estos actos son positivos

al conjunto de la sociedad este tipo de actos en qué beneficia que haya una parte de la sociedad que defienda el derecho a decidir es decir que defienda levantar fronteras en lugar de derribarlas esto es por lo que yo le pregunto si considera que es positivo para la sociedad el enfrentamiento que supondría ir
hacia un escenario de referéndum sobre la independencia eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

organizó una movilización ciudadana para reclamar de forma positiva y festiva una reivindicación absolutamente y democrática si me pregunta si una consulta pactada refrendada institucionalmente y legal sería positiva para euskadi la respuesta solo puede ser una sí sin duda

y a esa cuestión creo que lo mejor es que preguntará usted a ellos

que dirigentes del partido nacionalista vasco participen en un acto reivindicativo y pacífico sobre el derecho a decidir en cualquier caso y yendo a lo que usted también

usted confunde deliberadamente derecho a decidir con independencia usted vincula deliberadamente referéndum con enfrentamiento y usted sabrá por qué usted conoce la postura del gobierno y del lehendakari

suyas en numerosas ocasiones e insisto hay una ponencia que está trabajando sobre el autogobierno en el parlamento y he defendido en numerosas ocasiones

integrador que permita garantizar adecuar y avanzar sobre el autogobierno en euskadi que sea aprobado por este parlamento y
ratificado por la sociedad vasca y este es el procedimiento que yo he propuesto eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

representantes del partido nacionalista vasco participaron en esos actos y he señalado lo que dijo el portavoz del gobierno que efectivamente ese acto le parece positivo y bueno evidentemente aquí tiene que prevalecer

y cada cual puede defender lo que considere pero lo cierto es que el gobierno vasco se ha posicionado a favor de un acto concreto que reivindica el derecho a decidir de una parte de la sociedad para imponerlo al conjunto de la sociedad

por lo tanto la pregunta que yo le hago es si efectivamente este gobierno defiende el derecho a decidir y si es así cuándo y cómo y con qué apoyo

en práctica en qué fecha si van a seguir también engañando a la ciudadanía y si van a seguir practicando el doble juego derecho a decidir sí

el habitual doble juego político por lo tanto del partido nacionalista vasco porque el derecho a decidir sí existe pero no el que reivindica el nacionalismo vasco

del conjunto de la sociedad para decidir sobre los asuntos que le son de su competencia esta es la diferencia y cuando hay una parte de la sociedad que reivindica un derecho a decidir de solo una parte de la sociedad para decidir el futuro del país

asuntos que implican a toda la sociedad un gobierno democrático lo que tendría que decir es que eso existe el derecho a decidir entendido como ustedes entienden no existe existe el derecho a decidir del conjunto de la sociedad española y la sociedad vasca podrá decidir en función de sus competencias

o el futuro del modelo de estado o el cambio de modelo de estado o el cambio de la constitución española tenemos que decidirlo todos los ciudadanos españoles lo otro es una manifiesta y el gobierno vasco en lugar de decir que es un acto positivo lo que debería decir es que es un acto inviable porque es ilegal y es imposible llevarlo a la práctica

abierta y plural derribar fronteras en lugar de levantarlas eskerrik asko maneiro jauna lehendakari jauna zurea da hitza

creo que la realidad para usted es según cree usted que es o según dice usted que es

en este hemiciclo de setenta y cinco parlamentarios yo he dicho además de una ocasión que defiendo la institucionalización del derecho a decidir su procedimiento y su ejercicio desde un acuerdo

he declarado también que por encima de los planteamientos concretos de cada uno se asienta la necesidad de un acuerdo de país un gran acuerdo político

nuestras competencias a las necesidades de la sociedad vasca y la realidad de hoy usted señor maneiro sigue ahora mismo meneando la cabeza en sentido negativo lo cual es negar también esto que yo he estado diciendo en todas las intervenciones que pretendo darle respuesta

insisto adecuar nuestro autogobierno tanto en euskadi como en el estado y en europa usted señor maneiro pretende confundir dialogo con enfrentamiento y usted es usted señor maneiro quien prefiere

al del acuerdo yo prefiero el diálogo prefiero la negociación prefiero el consenso y prefiero el acuerdo y creo que la inmensa mayoría de esa sociedad también por cierto en escocia una consulta legal y pactada entre todas las partes se convirtió en un modelo de decisión democrático pacifico

un modelo tanto para escocia y reino unido como para el conjunto de europa por qué niega usted la posibilidad legal de que en el estado español y en euskadi

dónde se sitúa usted con la mayoría o en la absoluta minoría única en su representación eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

eskaerari buruz barrio jauna zurea da hitza muchas gracias presidenta buenos días a todos
lehendakari miembros del gobierno señoras y señores parlamentarios bueno estos días el pasado fin de semana el lunes también

de justicia en la prensa en relación con dos cuestiones distintas la verdad una la memoria dos mil catorce y las necesidades para dos mil quince y otra un documento interesante también solicitado por el consejo general del poder judicial a nuestro tribunal superior de justicia en relación con las necesidades

por lo que hemos visto a través de los medios de comunicación está bien claro que aquí tiene que funcionar para todos se desarrolle una maquinaria que empieza con las solicitudes del tribunal que tendrá que ser

con la actividad del ministerio de justicia pero también con el trabajo del gobierno vasco en relación con lo que pueden ser en ese periodo fortalecer

en este caso a través de la creación de diez juzgados

de apelaciones y en ese sentido sí que nos gustaría saber en un ámbito

se dan para fortalecer las capacidades de la justicia su trabajo y adecuarlo a las nuevas necesidades porque eso es lo que hemos visto que de eso se trata y eso también nos consta porque lo hemos hablado con miembros del órgano de gobierno del tribunal superior de justicia del país vasco en ese sentido lo que sí nos gustaría saber no en qué disposición porque

por cuestiones presupuestarias de competencia en relación con esas cuestiones vuelvo a decir en una maquinaria bien engrasada con otras instituciones en qué disposición se encuentra el departamento

para la creación de esos nuevos juzgados solicitados por el órgano

qué cómo valora usted esa solicitud es decir está también al tanto de ella han trabajado sobre esas claves yo creo que es importante

hablaban por un lado de la memoria y de los aspectos cualitativos

hablaba de un futuro en relación con fortalecer nuestra justicia en el país vasco y consideramos importante y esencial

disposición se está muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

señor barrio efectivamente como usted ha hecho constar el pasado veintidós de mayo la sala de gobierno del tribunal superior de justicia

acordó iniciar un procedimiento solicitando la creación de diez nuevas unidades judiciales en el ámbito de la comunidad autónoma y además una sección de apelación en la sala de lo civil y de lo penal del propio tribunal superior de justicia del país vasco es una solicitud importante las diez unidades judiciales son tres

cuatro del ámbito penal para las tres capitales y para barakaldo y después tres otras tres complementarias una de violencia contra la mujer para araba otro de vigilancia penitenciaria también para álava y otra mixta de primera instancia e instrucción que tendría su ubicación es una solicitud importante pero es una primera

el primer paso de un procedimiento que se pone en marcha a instancias del consejo general del poder judicial pero que tiene que seguir

en los artículos veinte y siguiente de la ley de demarcación y planta judicial para la acomodación de la planta judicial a las necesidades efectivas

y una intervención también de la comunidad autónoma afectada que en este caso somos nosotros es la comunidad autónoma vasca y el gobierno vasco en particular que recibirá

una solicitud por parte del ministerio para que emita un informe al respecto

el real decreto que dicta el gobierno central que finalmente pone fin al procedimiento no siempre se consigue que la propuesta inicial

y me refiero al dos mil catorce porque en los tres años inmediatamente anteriores por razones presupuestarias no se acordó la creación de ninguna nueva unidad judicial el año dos mil catorce hubo una propuesta por parte de la sala de gobierno

no se vio reflejado finalmente en el real decreto que puso fin al procedimiento por lo que se refiere a lo que tiene lugar este año mire el gobierno vasco efectivamente como usted apuntaba

estamos al tanto de la solicitud que ha formulado cuando desde el ministerio se solicite la información

un informe positivo emitiremos un informe positivo hablando respaldando la propuesta

culmina en el real decreto que ponga fin al procedimiento

efectivamente toda la solicitud entonces pondremos inmediatamente todos los mecanismos y todas las infraestructuras necesarias para que esa solicitud se pueda llevar a efecto y las unidades judiciales

puedan ponerse en marcha lo antes posible y adecuar la planta judicial a las necesidades objetivas de la prestación del servicio a la justicia a la comunidad autónoma gracias

erkoreka jauna barrio jauna zurea da hitza sí gracias presidenta con su permiso desde el escaño

agradecer la respuesta del señor consejero efectivamente hay noticias que a veces en la prensa salen escuetas

noticias que tienen que ver con el fortalecimiento de la justicia con el trabajo que tiene que hacer esos órganos judiciales en los próximos años con fortalecerlos a través de la creación de esos diez juzgados está bien explicado el por qué

sin perjuicio de la implicación de otros órganos de la administración de justicia

lo importante es saber y conocer desde luego el consejero aquí lo ha hecho a la implicación del gobierno vasco entendemos que cualitativamente es una noticia de calado

es algo que va a fortalecer la acción de la justicia y esperemos que esa maquinaria

y las instituciones correspondientes muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erkoreka jauna

eskerrik asko legebiltzar buru anderea señor barrio no tengo más que efectivamente ratificar

y asegurarle que en la tramitación de este procedimiento nuestra

no proviene solo del incremento de las personas en las capitales

en dos mil doce pero en tres ciudades y doscientos cuarenta y siete en dos mil catorce pero en diez municipios con la crisis el proceso de incorporación

sin hogar se está prolongando en el tiempo y cronificándose sabemos somos conscientes que la lucha contra la exclusión social más severa que es esta

se encuentra regulada y delimitada por la ley de servicios sociales que otorga a este gobierno la competencia legislativa y reguladora eta

amaitzeko ha nombrado usted la ley de servicios sociales y me alegra que lo haga porque en cuanto a las competencias nosotros creemos que ustedes tienen aquí algo que decir

pueden existir planes sectoriales siempre y cuando se justifique la necesidad estableciendo líneas de trabajo conjuntas interdepartamentales e interinstitucionales si a ustedes les parece que esta necesidad no está justificada pues ustedes verán

municipios a otros hay mucha diferencia de recursos hay mucha diferencia de atención y lo que le estamos pidiendo es que aprovechen que el tercer sector les

para que hagan una estrategia común para que la coordinen para que la lideren y para que hagan ese seguimiento y terminemos con esta problemática que evidentemente a nadie nos gusta esto es únicamente lo que le estamos pidiendo que ya aparece como una resolución como le he dicho del pleno del siete de noviembre esto es lo que le pedimos
solicitamos y esto es lo que esperamos que ustedes hagan eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea toña jauna zurea da hitza

hiru hiriburuetan eta udalerrietan en la ley de servicios sociales que hemos mencionado ambos se recoge que en los municipios de más de veinte mil habitantes contarán con servicios destinados al acogimiento de urgencia para atender situaciones críticas

y dicho esto sabemos que la inmensa mayoría de estos municipios no disponen de recursos suficientes para este colectivo para atenderlos debidamente

para que el consejo vasco de finanzas pudiera habilitar un fondo de provisión de diez millónes de euros para dos mil dieciséis concretamente

consejera este mes de junio el departamento de hacienda de la diputación foral de gipuzkoa se ha dirigido a la viceconsejera

a las campañas de promoción de ventas que se desarrollan por parte de distintos establecimientos comerciales con el gancho de no aplicar el iva en los productos ofertados

que estas campañas trasladan han consumidor una impresión equívoca sobre los impuestos

o perjudicial para la compra de productos y de lo que se puede prescindir sin problemas vienen a sugerir de hecho que aplicar

en una sociedad en la que la conciencia sobre el fraude fiscal no es aún todo lo robusta que sería deseable y donde todavía campan algunos sectores la oferta de las facturas con este tipo de campañas resultan especialmente rechazables porque incurren en un supuesto de publicidad engañosa y porque frivolizan una obligación cívica tan esencial

por todo ello señora consejera le preguntamos que medidas va a tomar su departamento para atajar las campañas comerciales que se realizan con el reclamo de no repercutir a los compradores

sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi señora corcuera como bien decía usted

y estas prácticas además de desafortunadas generan confusión confusión entre las personas consumidoras que puede dar lugar a entender que

aplicación o no dependiendo de lo que se desee en un determinado comercio

por esas dudas por el tipo de campañas y en segundo lugar por eso precisamente porque se traslada a la opinión pública una falta de rigor empresarial y una falta de rigor en las actuaciones que cada uno tiene de llevar a cabo en las obligaciones tributarias en definitiva ha quedado claro sin género de duda que

es un impuesto que graba al consumo en el consumo en la compra de cada uno y cada una de las personas que acudimos a realizar determinadas compras y que este es de obligado cumplimiento y cada una de las compras adquisiciones que realizamos está sujeta a iva digan lo que digan las mencionadas campañas

dejar de pagar o dejar a un lado la obligación de pagar el iva por tanto además de ese efecto pernicioso respecto a la concienciación ciudadana

no resultan veraces en definitiva estas prácticas tienen ese doble efecto negativo y como hemos advertido eso y además hemos recibido la solicitud de la diputación foral de gipuzkoa hemos puesto en marcha una mesa de trabajo porque no depende únicamente del departamento al que yo represento en la dirección de comercio sino también

tributaria con el fin de actuar de manera coordinada y de poner fin a este tipo de prácticas actuando en profundidad tomando una serie de acciones encaminadas

hemos invitado además a la autoridad vasca de la competencia a unirse al grupo de trabajo porque entendemos que es preciso intervenir en diferentes áreas concretamente en tres en primer lugar la fiscal

no la exigencia de abonar los impuestos legalmente establecidos información formación y sensibilización en materia de derechos y obligaciones de las personas consumidoras

de la competencia entre las distintas empresas en este caso dedicadas al comercio esas han sido las actuaciones puestas hasta este momento en marcha eskerrik asko eskerrik asko tapia

sí gracias presidenta consejera gracias por la respuesta

en marcha y esperemos que esos resultados de las acciones a desarrollar lleguen cuanto antes porque nosotros los socialistas entendíamos que su departamento tenía que tomar cartas

porque siendo cierto que en estas campañas publicitarias en ningún momento se deja de pagar el iva cuando se realiza una compra también es cierto que tienen efectos perniciosos para el esfuerzo

porque se destinan recursos públicos en campañas de educación cívica y de educación tributaria para concienciar a la sociedad sobre la importancia de cumplir con la legalidad en materia de fiscalidad y como nos jugamos en base a los ingresos públicos el disponer o no

estas campañas comerciales no solo tratan sin rigor el significado de la fiscalidad sino que además contrarrestan la eficacia de las acciones que en este caso el propio gobierno vasco

nos planteaba que el gobierno vasco estaba ya poniendo en marcha

de una materia en términos de información tributaria de conocimiento y de concienciación

para el próximo curso es verdad también que el sociómetro vasco de julio del dos mil quince venía a indicar que en el apartado sobre cultura democrática y en lo que respectaba la opinión sobre no declarar a hacienda todos los ingresos

decía ese sociómetro que un setenta y nueve por ciento lo consideraba inaceptable esa actitud por eso entendemos que respetando la libertad comercial en cuanto a lo que a campañas y promociones se refiere hay determinados asuntos que no pueden

por los efectos colaterales sobre la sociedad y en el caso además de la concienciación fiscal porque generan además de confusión están fomentando actitudes incívicas nada deseables por eso yo lo que espero es que esas acciones de la mesa de trabajo

que esas acciones lleguen cuanto antes porque estas campañas no son de un determinada época sino que van transcurriendo

y por ello hemos puesto en marcha la mesa de trabajo y no es una actuación puntual en la que se traslada a las empresas que eliminen esa definición de sin iva que también sino que de alguna manera pongamos en marcha actuaciones sistemáticas que nos lleven a esas tres actuaciones concretas que debemos garantizar y exigir el cumplimiento del abono de la parte fiscal de los tributos

y sobre todo que tenemos que actuar de tal forma que se garantice que todos trabajan en las mismas condiciones

actuar de forma concreta sobre esas campañas publicitarias vamos a actuar de forma más estructural y más sistemática eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

en el ámbito de nuestra comunidad el derecho a las prestaciones y servicios sociales

un elemento diferenciador que esta ley aporta respecto a la ley anterior además incorpora los instrumentos de gestión y coordinación necesarios

el pleno cumplimiento del objetivo de la ley que como decía es promover y garantizar el derecho a los servicios sociales

en dicho catálogo se clasifican los servicios sociales de atención primaria atención secundaria y prestaciones económicas

que define los aspectos que cada servicio y prestación económica deben contener el decreto ciento cuarenta y cuatro barra dos mil once de veintiocho de junio

la teleasistencia como un servicio técnico de apoyo e intervención social que permite a las personas usuarias a través de la línea y con un equipamiento de comunicaciones e informático específico disponer de un servicio de atención permanente las veinticuatro horas del día y todos los días del año atendido por personas específicamente preparadas para dar respuesta adecuada a situaciones de necesidad social o de emergencia definición que también se recoge en el documento de decreto de la carta de servicios donde además se especifica que para cumplir el servicio se debe contar con un servicio de contacto

con registro de datos la identificación de los usuarios atención personal para garantizar en el caso de necesidad la presencia en el lugar de las personas

y social de las personas con falta de autonomía y que puedan necesitar supervisión ofrecer conexión permanente con las redes asistenciales

y ofrecer soporte a la red sociofamiliar de apoyo que asume el cuidador familiar de las personas usuarias tenemos una definición muy clara para el servicio de teleasistencia también es muy claro con qué medios debe contar el servicio y también son muy claros los objetivos del servicio de teleasistencia

este servicio se presta por encomienda de gestión a través de osatek

este servicio osatek en su memoria anual dice sobre el apartado a la teleasistencia

a partir de ahora betion es el resultado de la cooperación entre el departamento de salud

para la prestación de un amplio conjunto de servicio sanitarios y sociales de forma no presencial y yo me pregunto en la definición del servicio de teleasistencia en los objetivos

en la carta de servicios dónde aparece que desde el servicio de teleasistencia se tengan que hacer servicios sanitarios le pregunto señor consejero porque no lo hemos visto además osatek en sus conclusiones en el apartado de la memoria que hace dos hojitas que hacen referencia el servicio de teleasistencia dice

centrado en la persona cuyo aspecto fundamental es atender sus necesidades sociales y sanitarias de forma coordinada tanto en su vertiente preventiva como en la asistencial

como herramienta asistencial la teleasistencia atesora un desarrollo casi ilimitado y desempeña un papel primordial en conjunción con otra serie de medidas ayuda a domicilio productos de apoyo para el autocuidado la educación al paciente fomento de la participación social mejora en la accesibilidad a la vivienda

etcétera señor consejero cree usted que estas conclusiones que recoge osatek en su informe anual

con la definición de la teleasistencia que se da tanto en el decreto ciento cuarenta y cuatro barra dos mil once o en el decreto de la cartera de servicios cree usted que coincide qué entiende usted señor consejero por desarrollo potencial casi ilimitado

dónde se incluye la telemonitarización dentro del servicio de teleasistencia

ni en la cartera de servicios a qué obedece esta inclusión señor consejero estamos hablando de servicios sociales servicios sociales como es el caso del servicio de teleasistencia

muy sensible muy vulnerable y nos da la impresión de que aquí no coincidequien está o tiene la encomienda

ley de servicios sociales el decreto la cartera de servicios que define claramente la definición el objetivo y los medios

su criterio y si realmente cree usted que coincide el objetivo y las conclusiones que saca osatek

de la ley y la cartera de servicios eskerrik asko

los objetivos fijados en ese decreto son cuatro favorecer

e integración en el entorno familiar y social habitual a personas que por limitaciones en su autonomía o por encontrarse en situación de riesgo de aislamiento social pueden requerir una atención urgente

y una o una supervisión frecuente o constante tanto en su domicilio como fuera del mismo evitando el ingreso innecesario en servicios

ofrecer una atención integral a las personas usuarias a través de una conexión permanente con las redes asistenciales que mejoren su calidad de vida y refuerce su sentimiento de autonomía y seguridad en el domicilio proporcionar

y en cuarto lugar ofrecer apoyo al entorno socio familiar

a la vista de la definición y de los objetivos que se fijaron en aquel decreto regulador para el servicio público de teleasistencia tengo que afirmar que

el artículo veintidós de la ley doce barra dos mil ocho de cinco de diciembre de servicios sociales

vasco de servicios sociales el servicio de teleasistencia declarándose al mismo

el artículo cuarenta y seis de esta ley de servicio sociales establece que la atención socio sanitaria

que por causa de graves problemas de salud de salud o limitaciones funcionales y o de riesgo de exclusión social necesitan una atención sanitaria y social simultanea coordinada y estable ajustada al principio

la teleasistencia de servicios sociales se enmarca en un sistema global de prestación de servicios de atención en el domicilio para favorecer la permanencia e integración

familiar y social habitual de las personas que ciertamente es lo que desean y ofrece una conexión permanente con la red social asistencial una atención integral a las personas usuarias que mejoran en definitiva su calidad de vida y refuerza

y de seguridad en el hogar el desarrollo de dicho sistema permite prestar un servicio integral para las actividades no presenciales tanto del ámbito social

en relación a la atención socio sanitaria la cooperación entre el departamento de empleo y política sociales y el departamento de salud se articula en torno

sanitarios y sociales de forma no presencial y esto se articula a través de un proyecto denominado osarean que cuenta con un centro de servicios multicanal

cada vez más los servicios y este tipo de servicios en particular son más duales son sociales y son sanitarios al mismo tiempo

son los siguientes ofrecer en primer lugar a la ciudadanía la disponibilidad de canales de interacción no presenciales con funcionamientos veinticuatro por siete título por cierto de un libro que recomiendo que está de actualidad

a los servicios en segundo lugar potenciar modelos de atención y cuidados innovadores en el domicilio de las personas y potenciar el autocuidado en tercer lugar promover estilos de vidas más saludables entre la población personalizando en la medida de lo posible los mensajes de acuerdo a la edad estado de dependencia y estado de salud de cada persona conseguir

y personas en situación de dependencia o de aislamiento social que permita identificar situaciones de riesgo y actuar en ellas y en este punto tengo que matizar que se ha dotado al servicio de una dimensión socio sanitaria de la que carecía antes de que pasara a ser competencia del gobierno vasco en julio del dos mil once con una coordinación creciente desde el punto de vista

por lo tanto tampoco entiendo a veces por qué se hacen

sirva de ejemplo algunas modalidades de derivación realizadas consejo sanitario consejo telefónico a cargo del personal de enfermería de osakidetza mil seiscientos veintiuno derivaciones en mayo de este año

conocido como usted ha dicho como betion cumple su cuarto año de andadura

que es quien gestiona el servicio de consejo sanitario disponible para toda la ciudadanía como no puede ser de otra manera trescientos sesenta y cinco días al año

a la hora de solicitar una recomendación sobre cómo actuar ante un problema de salud si las personas usuarias de teleasistencia tienen una consulta sobre salud solo tienen que pulsar la medalla para que se derive la llamada al consejo sanitario de osakidetza en las llamadas de seguimiento mensuales

de la posibilidad de ser atendidas por personal sanitario ante cualquier problema de salud derivando dicha llamada

lo que facilita ciertamente a los usuarios este servicio

desde este servicio de teleasistencia se apoya la gestión de la cita previa

a las personas usuarias mediante la pulsación simplemente del medallón

bien de su centro de atención primaria de salud con personal médico y o de enfermería cita telefónica o cita personal con personal médica y o de enfermería la central de tele asistencia

un grupo de personas usuarias ha recibido un detector de caídas integrado en el pulsador que permitirá realizar un análisis de dichas acciones

en las derivaciones de llamadas se realiza un correcto filtrado hacia la organización adecuada

es un avance ya que al inicio del servicio todas las pulsaciones de los territorios de araba y gipuzkoa desembocaban directamente en sos deiak sin ningún filtro previo

de lo que debe cumple con la ley eskerrik asko toña jauna